lo digo también por diferenciar las propuestas que construyen de

de construcción el problema de la vivienda de los desahucios y de los lanzamientos de los alquileres se ha agravado en los últimos años en euskadi son tres mil cuatrocientos treinta familias las desahuciadas en los tres

en el año dos mil diecinueve ochocientos seis de ellos fueron derivados de la ley de urbanos es decir de los alquileres

resultantes de la ejecución de una hipoteca ese es el gran

y la especulación en el sector del alquiler

sanitaria y a pesar de esa suspensión de los desahucios durante el primer estado

ahora mismo los hogares están muchos hogares están sufriendo caídas de ingresos significativos han perdido el empleo y están en muchos casos en riesgo de perder

veinte esta crisis va a volver a caer

vulnerables que han sido también las que han sufrido de forma más rigurosa la pandemia y las medidas del confinamiento porque volvemos a decir no es lo mismo sufrir

humilde y esto no hace más que constatar la necesidad que tenemos de ayudar y sobre todo de proteger a las miles de familias que se han visto afectadas por esta crisis por las rentas cada vez más grandes

más grande y que tienen muchas veces que decidir entre pagar el alquiler o pagar los servicios básicos y la alimentación según el informe del mercado de la vivienda en españa entre el año catorce y diecinueve

y la renta anual del hogar en más de uno coma cinco veces la mediana de todas las capitales de provincia en gasteiz también se superaba la media

administración que pretende garantizar el derecho a una vivienda tiene y tenemos una ley de vivienda potente para hacerlo

que tenemos que facilitar al máximo los servicios que se están prestando

que creemos que hemos hecho un esfuerzo de acercamiento desde nuestra proposición inicial que directamente

de ventanilla única podemos buscar el nombre que queramos

en esa propuesta a realizar una evaluación de las diferentes políticas que he descrito y que seguramente algunas de las personas que me van a suceder en la palabra también hablarán

de cómo están funcionando esos servicios decíamos un mes pero también evidentemente estábamos abiertos si es por negociar al plazo a llegar un acuerdo y que dicha evaluación además

propuestas de mejora por parte del propio departamento de vivienda por parte de kontsumobide por parte del departamento de justicia por parte en definitiva del gobierno vasco

o más o menos razones empíricas económicas jurídicas legislativas

al gobierno que estudiara que hiciera un estudio para estudiar la viabilidad de la ventanilla única en el seno de la materia de vivienda para además dentro de ese estudio incluir una memoria de servicios económica y de personal

de crear este servicio no ha sido posible beste aukera galdu bat da nire ustez

que te rondaré morena porque saben ustedes por qué pues porque

y se han dedicado recursos a viviendas de vpo en régimen de venta y eso ha sido un fallo grandísimo pues se han generado diferencias entre a quienes les tocaba la lotería del sorteo de la

pero no me voy a repetir en esto para nosotros es importante destinar recursos al contenido directo es decir perdón al cometido directo es decir que redunden directamente en los ciudadanos inflando más la administración con chiringuitos que sí que ustedes me van a decir

o movilizar viviendas privadas para alquilárselas a quienes tienen dificultades con el pago de su vivienda o simplemente para acceder a una vivienda lo hemos oído cantidad de ocasiones al consejero

y tienen necesidades para el pago de su vivienda pues señores lo que yo propongo

actuemos con urgencia para que en cuanto detectemos que alguien está con un problema

tengamos que intervenir intervengamos antes de que se la quiten no dejemos que se produzca el desahucio por impago ayudémosle a pagar lo que es un derecho subjetivo la vivienda hasta que hagan bien los deberes y tengamos un parque de vivienda pública que soporte

es más quiero hablar de algo que a nuestro grupo le preocupa y creo que a algunos de aquí también cómo vamos a dar la vuelta a la pirámide poblacional

en otra ocasión que tendremos tiempo seguro por qué me he visto en la necesidad de crear otro ente unificado de vivienda pues porque la mayoría de los ciudadanos

y quiero dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de base que llevan unos años estrujándose y rompiéndose la cabeza trabajando para sacar para transmitir las necesidades de los ciudadanos que van perdiendo su vivienda o que están en peligro de perder su vivienda y

no van a contar con nuestro apoyo porque no podemos inflar las administraciones con estructuras que suplanten la labor

los servicios de justicia que para quienes no tienen recursos están los abogados de oficio

las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales de los servicios de base tienen ya mucha carrera en esto y les apoyan y les ayudan incluso tenga en cuenta que hay administraciones públicas como los ayuntamientos que utilizan a sus servicios jurídicos para ayudar

en cuestión del ayuntamiento de irún ya tenemos un ente vasco para arbitrar con los conflictos entre inquilinos y propietarios bizilagun ha nombrado el representante de bildu ahí es donde salta la alarma un inquilino no puede hacer frente al alquiler no dejemos que se llega a los juzgados

a nuestros ciudadanos en problemas informemos a quienes tienen dificultades muchas personas desconocen que pueden acudir a los servicios sociales de base para explicar su situación agilicemos los trámites si algo tenemos que reforzar son estos servicios sociales de base para que previendo

estemos preparados porque saben ustedes y no nos va a pillar de nuevas que

por lo tanto reforcemos esos servicios sociales de base para que puedan atender

lo eminente y lo necesario ahora mismo lo urgente es ayudar a quienes tienen dificultades para pagar sus viviendas y lo siguientes es ponernos a construir viviendas de alquiler público en este sentido

se plantea la necesidad de crear un servicio unificado de orientación y

habitacional información preventiva y asesoramiento en casos de

hipotecario prevención de abusos en el mercado de la vivienda y asistencia a las personas incursas en situaciones

en relación a esta cuestión debemos señalar que efectivamente las funciones mencionadas se encuentran ejercidas por diferentes departamentos de la administración general de nuestra comunidad autónoma de euskadi en primer lugar el departamento de igualdad justicia y políticas sociales ofrece el servicio de mediación hipotecaria que como he mencionado anteriormente fue puesto en marcha siendo la hoy

mendia la consejera de justicia por otra parte el departamento de turismo comercio y consumo a través de kontsumobide instituto vasco de consumo informa y orienta a las personas consumidoras en temas de consumo como el de vivienda también en relación a sus derechos y obligaciones

en la pasada legislatura por el que era entonces consejero en la materia alfredo retortillo el departamento de planificación territorial

vivienda y transporte ofrece el servicio bizilagun que es un servicio público

gratuito que tiene como objetivo entre otros ofrecer instrumentos útiles para solucionar desencuentros y desacuerdos en las comunidades de vecinos o en las relaciones entre

arrendatarios por otro lado se ofrece desde este mismo departamento en el acceso a las viviendas de protección pública o asimiladas a personas afectadas por un desahucio y en determinados casos del acceso directo

han traído a este pleno además de ser repetida aboga por la creación de un servicio unificado de orientación y de atención integral en materia de vivienda siguiendo el principio de ventanilla única

que esas funciones ya se están desarrollando en la actualidad en los diferentes departamentos mencionados

por la carga en tiempos esfuerzos recursos económicos y personales que ello supone cuando ya como decía se está brindando en la actualidad a través del trabajo conjunto

el análisis coste beneficio social y económico no se superaría la prueba en el momento actual

en el futuro debemos de recordar que desde el departamento de vivienda que dirige el señor arriola hoy aquí presente se ha trabajado ya desde la anterior legislatura para reforzar dichos recursos y fortalecer así la gestión de las viviendas de protección pública o asimiladas en régimen de arrendamiento el programa gaztelagun y la gestión de la prestación complementaria de vivienda que actualmente gestiona lanbide

es además el convenio de colaboración que antes le he mencionado entre el consejo general del poder judicial la administración general de la comunidad autónoma y eudel el instrumento que permite

un lanzamiento judicial de vivienda de personas de especial vulnerabilidad tal y como se solicitó en esta misma cámara en el debate de esta misma iniciativa

dicho convenio ofrece un protocolo de actuación que desarrolla la forma a través de la cual con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por impago de las rentas correspondientes

vulnerabilidad además se da traslado a los servicios sociales del correspondiente ayuntamiento siempre con respeto a las normas de procedimiento y todo lo relativo

carácter personal para que se examine la situación y de común acuerdo entre las tres instituciones que firmaron el convenio proceder a actuar en función de la situación específica generada bien formulando una propuesta de intervención por parte de los servicios sociales municipales bien con la tramitación de alguna ayuda o prestación social bien con la derivación a otros servicio social o bien declinado la misma por considerar que las importantes no permiten concluir que se trate de una situación

o que haya sido respondida por los medios de los que se disponen en fin

al facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos y la realización de actividades de utilidad pública

diferentes departamentos del gobierno vasco ya se están trabajando en esta cuestión y existe una propuesta además muy avanza de colaboración

alternativa considero por tanto y a la vista de los datos de los que disponemos que esta situación

tal y como ustedes lo están proponiendo con los objetivos y con las necesidades que están de alguna manera sí me gustaría recomendarles que solicitaran los datos correspondientes a los lanzamientos en los últimos tiempos para que se den cuenta que precisamente a través del trabajo que se ha venido realizando desde el departamento de vivienda desde otros departamentos de este mismo gobierno y también gracias al convenio de colaboración suscrito

eudel y el propio gobierno vasco se han mejorado los instrumentos se actúa de manera mucho más eficaz y eso evidentemente se demuestra en los resultados que como digo yo creo o le recomendaría que los solicitaran porque eso demostraría que efectivamente

no solo está en marcha sino que se hace de manera eficiente tal y como le he apuntado eskerrik asko

egon zen criticando que esto fuera un nuevo chiringuito le aclaro que la propuesta usted

igual que hice en la pasada legislatura con una regulación unas normas un personal laboral de funcionarios un presupuesto asignado por tanto puede estar de acuerdo o no pero no casa con la definición de chiringuito

soy contumaz seguiremos presentando iniciativas si no iguales parecidas o similares para avanzar en la política de vivienda en este país eskerrik asko

gracias mire resulta que por la experiencia

personas que se encontraban en dificultades en el pago de su vivienda la experiencia me ha hecho darme cuenta de que el problema no era que el servicio no estuviese en marcha sino que

de base le vuelvo a repetir el problema es que en circunstancias económicas extremas mucha gente se ve abocada a

y lo que sucede es que desconocen completamente cómo es el uso de los servicios sociales de base por lo tanto no creo que la necesidad sea tanto la de generar

un ente que vaya a gestionar o que vaya ayudarles sino que dar a conocer a las personas a los ciudadanos que pueden tener una solución y que se les puede ayudar que no estoy en contra de que se pueda

en las oficinas en los servicios sociales de base por lo tanto lo que hay que hacer es implementar con más ayudas para que esas personas

están teniendo problemas debido a una crisis económica creada por una pandemia o anteriormente una crisis

a las personas para que redunden directamente en ellos y la verdad que muchas veces me exalto hablando de este tema porque me da la sensación de que generamos más gasto sin que redunde directamente en las personas y lo que necesitan los ciudadanos es que les ayudemos a pagar esos alquileres y que les ayudemos a salir

entonces si usted se ha sentido ofendido cuando he llamado chiringuito es porque creía que realmente lo que se tiene que destinar el dinero es al fin

egingo dut ante situaciones excepcionales hay que poner en marcha medidas excepcionales creo que se venía funcionando muy bien evidentemente

que estamos padeciendo ha hecho que algunas situaciones evidentemente se hayan agravado pero mire es curioso porque si usted coge o solicita consultapor ejemplo el último informe disponible relativo al segundo trimestre del dos mil veinte del consejo general del poder judicial sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales se dará cuenta que el número de lanzamientos totales practicados en españa en el segundo trimestre del dos mil veinte

donde se aplicaron medidas excepcionales el escudo social que desde el gobierno de españa se aplicó para que los más débiles no sufrieran de manera más cruda esa crisis

dentro de ese escudo social evidentemente había otro tipo de herramientas como por ejemplo el de solicitar la suspensión extraordinaria

del dos mil veintiuno pero por ejemplo si mira otros datos por ejemplo los que facilita la sección de estadística judicial del consejo general del poder judicial hace una continua referencia a la evolución de los lanzamientos y cuando habla de euskadi dice que es

totales efectuados en españa desde el dos mil trece al dos mil veinte teniendo en cuenta nuestro peso poblacional si hace usted la comparación yo creo que es un dato

son eficaces y yo no le voy a negar que su propuesta no sea estudiable me parece incluso interesante

interesante pero creo que a día de hoy las herramientas que ya tenemos encima de mesa están funcionando bien

si la situación empeora se puedan establecer otra serie de instrumentos incluso su propuesta pueda estudiarse pero creo que en estos momentos y ya no es una cuestión únicamente de plazos creo que es una cuestión de eficiencia no cabía el poner el servicio que ustedes proponían en fin claro evidentemente ustedes no dicen que no se esté haciendo es que es incontestable que se está haciendo y que además se está haciendo bien y que además otros partidos han sido también

las que sean y evidentemente también podremos decir que ha habido partidos como el partido socialista que ha contribuido especialmente a fortalecer las políticas destinadas a alquiler de vivienda en euskadi y es innegable y en esta misma cámara aprobamos en la pasada legislatura una iniciativa creo que por práctica unanimidad a través de la cual se instaba al gobierno a que todas las viviendas de promoción pública

fueran todas en régimen de alquiler en cualquier caso en fin yo todas las propuestas evidentemente que vengan de su mano relativas a esta cuestión no solo bienvenidas sino estudiadas con detenimiento como se ha hecho con esta iniciativa se lo puedo asegurar que tanto desde el gobierno como desde nuestro grupo parlamentario se ha estudiado se ha analizado muy seriamente su propuesta

en esta legislatura podamos tener iniciativas que incluso aporten una mayor frescura a las mismas y sean novedosas para poderlas estudiar y no estar dando vueltas a iniciativas que ya debatimos en la pasada legislatura y para terminar a la señora del partido popular simplemente un apunte apunte ustedes usted ha hablado de las viviendas vacías en régimen

la atención porque precisamente fue el partido popular en el gobierno de españa quien puso un recurso ante el constitucional a la ley de vivienda aprobada en este

en todo lo relativo al articulado que hacía referencia a la vivienda vacía por tanto mire yo le invitaría a que hablara con sus compañeros para que en lo sucesivo efectivamente apoyen a este gobierno en todo lo relativo

de alquiler y especialmente las que están dirigidas a aquellos sectores sociales que son más vulnerables eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

la propuesta no de ley que presentamos ante este parlamento tiene que ver con una cuestión que preocupa ampliamente a toda la sociedad a la sociedad vasca a la sociedad española

que tiene que ver con el fenómeno de la ocupación ilegal la ocupación ilegal ilegítima de viviendas la propuesta tenía como tiene como finalidad digo tenía por lo que diré a continuación pero tiene como finalidad

legislativos centrales a que se modifique la legislación nacional para hacer efectivo realmente el derecho a la propiedad en este caso el derecho a la vivienda los derechos no son nada sin las garantías se ha dicho esto

y de esa manera hacerlo efectivo entendemos que hay una necesidad de clarificar ciertos aspectos sobre todo de índole procesal

creíamos que era importante poner el foco el asunto en esto me gustaría yo deseaba además tener un debate sensato sereno informado con todo el resto de grupos parlamentarios sobre esta materia y lo podamos tener pero hoy al final la enmienda de transacción que han firmado

de esta cámara los del gobierno eh bildu y también elkarrekin podemos izquierda unida

en otro elemento que tiene relación o puede tener una cierta relación con el fenómeno de la ocupación

lo que hace simplemente es basar que el fenómeno de la ocupación es por culpa o es consecuencia de que no hay un acceso a la vivienda universal

el debate pasa a ser el tema del derecho a la vivienda que por otra parte como diré en el segundo turno nosotros no tendríamos ningún inconveniente

de un texto de las características que han presentado los grupos pero en otro debate en un debate sobre el acceso a la vivienda y el desarrollo de la ley de vivienda que se aprobó también en este parlamento vasco pero bueno la mesa ha aceptado en uso de sus competencias muy generosamente interpretada siempre por el tribunal constitucional ha asumido entendemos que

pues ha asumido sin embargo que merece la pena pues eso aceptar una enmienda que en realidad lo que hace es hablar de otro tema que yo entiendo que se aleja

no obstante vamos a defender nuestra propuesta y en el turno de réplicas pues haremos hincapié en algunos de los elementos y propuestas que también incide

mire el derecho a la propiedad es esencial en toda sociedad moderna el propio estado

hay miembros juristas sobre todo interesados en la teoría del estado que valora

el estado surge en realidad para proteger la libertad para proteger la libertad y la seguridad y el derecho a la propiedad aunque

es una manifestación de la libertad y de la seguridad de las personas y es una manifestación precisamente de esa libertad lo que hace o lo que hizo necesario que en el estado aquí podríamos hablar de las teorías

garantizara precisamente este derecho se trata simplemente de la garantía del ejercicio de un derecho de carácter fundamental es cierto que la constitución española no lo incluye en el elenco por ejemplo de derechos que tienen que están sometidos entre otras cosas a desarrollo mediante ley orgánica y recurso de amparo pero sí que es cierto que en virtud

que el artículo uno el protocolo adicional primero ya saben ustedes que reconoce como derecho fundamental

al tribunal europeo de derechos humanos en los últimos tiempos sin embargo lo cierto es que la sociedad española ha vivido una situación en la que

de viviendas concretamente de inmuebles se ha visto conculcado se ha visto afectado se ha visto pisoteado en demasiadas ocasiones la ocupación ilegal de viviendas ha aumentado según datos del propio ministerio del interior un cincuenta y ocho por ciento en los últimos años hemos pasado hasta doce mil casos denunciados en el año dos mil dieciocho solamente en lo que llevamos de año hay hasta casi ocho mil casos de denuncias nuevas es cierto que

en cuanto recuperemos la normalidad que esperemos que sea pronto y por cierto con todas las garantías constitucionales volveremos a vivir esta situación se estima que en españa

aunque el cálculo o el número podría quedarse corto precisamente porque hay casos que no se denuncian hay casos que no se denuncian y casos que tristemente como veremos no pasan por los órganos judiciales

por otras vías que creemos que no son adecuadas para abordar correctamente el problema de la ocupación y a mí me gusta hacer un debate ciertamente

hay que distinguir tres cuestiones hay que distinguir tres cuestiones en primer lugar uno de índole jurídica que tiene que ver con las garantías del derecho de la propiedad las garantías del derecho a la propiedad que y la respuesta jurídica que tiene que dar el ordenamiento quizá no todo deba tener una respuesta penal evidentemente hay delito el delito de usurpación puede haber una situación de allanamiento de morada

o toda reacción del ordenamiento jurídico esto es así es cierto que en virtud del principio de intervención mínima del derecho penal que toda constitución reconoce la segunda distinción

que me gustaría hacer también y llamar su atención sobre ella es una que tiene si quiere naturaleza social o política porque

hay una situación de desahucio una situación de desahucio y por tanto hay una situación de vulnerabilidad de necesidad y de personas afectadas por un desahucio

y de situaciones digo afectadas por un desahucio que

atendidas por los poderes públicos y en esto nosotros estamos de acuerdo pero aparte de las situaciones de los desahucios también tenemos situaciones de ocupaciones ilegales

todo nuestro reproche y que deben merecer todo reproche por parte de los poderes públicos y en tercer lugar y en tercer lugar es necesario dentro de las ocupaciones ilegales

hay ocupaciones ilegales que se llevan a cabo a través de grupos organizados a través de grupos delincuentes organizados para sacar un rédito económico y hay ocupaciones ilegales que se llevan a cabo por parte de lo que se suele llamar grupos antisistema quizá haya cada vez menos antisistema porque están dentro del sistema quizá con la finalidad también de destruirlo desde dentro pero esa es la división histórica contra

hay que actuar en defensa de la ley de la propiedad privada la ocupación debe ser objeto de un reproche por parte del ordenamiento y por parte de los poderes públicos si no atajamos este problema de una manera correcta ponderada desde la norma desde el derecho al final llegaremos a situaciones en las que los particulares se van a acabar tomando

por su mano y esa es la situación a la que no queremos llegar vuelvo a recordar otra vez a los clásicos el estado comienza como una respuesta para poner orden ante esa situación de desorden absoluto en el que cada uno se toma la justicia por su mano

si el estado es incapaz de poner orden si es incapaz de garantizar la propiedad y la seguridad volveremos al llamado estado de naturaleza

no resulta agradable vivir tenemos casos en bilbao hemos tenido casos de una señora mayor que se ausenta de su casa luego vuelve y se encuentra que tiene la vivienda ocupada y al final han tenido que ser los vecinos los que han intervenido me dirá oiga es que usted también esto es un caso excepcional y tal bueno es un caso

pone de relieve una situación que hay que atajar y que no debemos permitir

que resolver en este caso la propia solidaridad vecinal porque esto acaba afectando a la convivencia

que acaba degenerando en narcopisos o en sitios donde se acaba vendiendo también o se acaba traficando también con otro tipo de sustancias

eso es una realidad que se da en ciertas circunstancias y eso es lo que pretendemos nosotros evitar existe por tanto la necesidad de modificar el ordenamiento jurídico recientemente después de un informe del defensor del pueblo tanto la fiscalía como la secretaría de estado de interior emitieron sendas instrucciones una de ellas para ver el papel que había de tener la fiscalía y la manera en la que debía de actuar

insisto complejas porque son variadas además hay situaciones de desahucios hay situaciones de ocupaciones ilegales de entre las ocupaciones ilegales hay toda una tipología y también una instrucción

de interior relativa a los protocolos que ha de seguir la policía en estas situaciones pero en todo caso en todo caso esto se ve como algo insuficiente se ve como algo insuficiente sobre todo porque el ordenamiento jurídico es incapaz

de proceder a una resolución relativamente rápida del problema conviene destacar que en el ámbito comparado

en ciertos estados vecinos en los que siempre nos queremos reflejar

no exentos de garantías sino simplemente rápidos para poder recuperar un bien como puede ser la vivienda

tienen su casa pero es que además pueden vivir de unas viviendas que tienen en propiedad

que garantizan a los ciudadanos la recuperación legítima de su propiedad en un plazo muy breve de tiempo se han producido ciertos avances como decía antes pero

la proposición que nosotros hacíamos en serio lo digo y lo repito otra vez

que pudiera suscitar la adhesión quizá de otros grupos luego de una transacción yo creo que hemos demostrado que

simplemente planteaba una cosa que no es más que la aplicación del ordenamiento jurídico pero es una declaración política

en manifestar el compromiso con el derecho de propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal y en segundo lugar instar tanto al gobierno de españa

los grupos parlamentarios que tienen representación en este caso en las cortes generales a que lleven a cabo este tipo de una ley o que aprueben sobre todo en este caso una modificación de la legislación los aspectos procesales especialmente

de la propiedad de una persona a la propiedad privada en esta cámara la verdad es que hay ciertos

una bancada la bancada norte la bancada sur la bancada oeste se levantan no como digamos la palabra empresa hay una bancada que de repente se despierta del sueño parlamentario si hablamos de temas de euskera hay otra bancada que de repente espabila si hablamos del tema de ocupación parece que también hay otra bancada

vuelvo a insistir nosotros no teníamos ningún inconveniente en haber aprobado una resolución muy similar a la que ustedes han planteado en la transacción muy similar

se deriva simplemente de que no existe un acceso de todos a una vivienda no hombre no es un fenómeno más complejo nosotros estábamos de acuerdo en discutir eso pero bueno han decidido

esta enmienda o esta transacción que en el fondo lo que supone en sí mismo es un fraude al propio debate porque desviamos de atención de lo que es la ocupación con lo que es el tema de la vivienda social por supuesto que hay que desarrollar la vivienda social por supuesto que hay que desarrollar la vivienda además en régimen de alquiler por supuesto que se tiene que hacer teniendo en cuenta también los ingresos y la situación muchas veces de desamparo en la que se encuentran muchas personas pero es una tendencia típica que existe

por lo visto en el ámbito ya parlamentario del día a día que consiste oiga no discutir el tema y presentar una enmienda

yo creo que la enmienda que hemos planteado es suficientemente razonable y además

el grupo o los portavoces del partido nacionalista vasco ya nos han hecho llegar que la proposición de ley que hemos planteado

cuenta en principio con una opinión muy favorable por parte del partido nacionalista vasco que sin embargo aquí pues prefiere en este caso

me puede parecer bien en otro contexto y no tengo ningún inconveniente que lo discutamos en otro contexto pero yo creo que desvirtúa

ha hecho usted un ejercicio de bueno de no sé si de buenismo o de bonitas

vasco pp ciudadanos y vox han presentado esta iniciativa o similares en distintos parlamentos autonómicos en el congreso de los diputados

como el de bilbao y eran iniciativas que nacieron rancias pero envejecieron mal además

con vox la pelea en el día de hoy la ha ganado ha presentado usted la iniciativa antes pero hasta ahí se va a quedar

que generan por cierto sus políticas y de agitar fantasmas inexistentes para tapar las vergüenzas de un sistema

como es el derecho a la vivienda y por tanto rechazamos profundamente tanto su iniciativa como el espíritu de la misma

aún están frescas en la memoria las víctimas de la crisis del boom inmobiliario que produjo en el año dos mil ocho

popular y ahora mismo como decía en la iniciativa anterior estamos ante una nueva crisis económica fruto de una crisis sanitaria

un triple enfrentamiento al virus a la crisis al posible desempleo y a quedarse en la calle y eso es lo que tenemos que impedir

esa es la auténtica vergüenza de españa su partido no ha presentado ni una sola iniciativa en torno a ese tema

es un escándalo y ha merecido además la condena del comité económico y social de las naciones unidas y además voy a decirlo aquí acogemos con esperanza gracias a la lucha de la pah

y de muchos partidos y de otros organismos del anuncio por parte del gobierno de coalición de una nueva ley de vivienda en el estado español en el que se van a regular los alquileres que son los que ahora mismo están llevando a la gente a la calle y esperemos que también se avance en la protección de los inquilinos vulnerables con riesgo de ser desahuciados espero

daukagu sesenta mil más de sesenta mil solicitantes de vivienda veinte mil personas de esas sin ingresos

relativamente rápida más allá de las cifras los datos de vivienda que también de vivienda vacía que se han dado que son mayores precios del alquiler de más de mil euros de media

un salvo un falso debate sobre otro falso nombre que es el de la ocupación sabe usted que las denuncias por ocupación en euskadi en bizkaia araba y gipuzkoa se han reducido en lo que va de año respecto a dos mil diecinueve según el ministerio del interior

su iniciativa porque en este debate de la ocupación y se ha dicho ya de una forma interesada y manipuladora desde la derecha o las derechas

inocular miedo a la población y caminar hacia su único objetivo que es legislaciones más punitivas más duras contra los pobres en definitiva como se ha dicho

de ingresos ustedes confunden deliberadamente a quien ocupa un inmueble en desuso es decir quien comete

con quien entra en una casa habitada ya sea primera segunda o tercera

artículo doscientos dos punto uno del código penal la ley ya garantiza

residencia ya lo hace y lo sabe perfectamente nadie se va a por el pan tampoco en bilbao

mentira nadie la policía y la justicia actúa si alguien te entra en casa

en cambio si estamos ante un inmueble en desuso apoderarse del mismo se trata de un delito de usurpación

artículo doscientos cuarenta y cinco punto dos del código penal y aquí sabe usted perfectamente y seguramente mejor que yo que hay dos vías la vía penal que es algo más larga pero que acaba en el noventa y nueve por ciento de los casos en desalojo y la vía civil creo que le sonará de algo la ley cinco barra dos mil dieciocho que permite desalojar

y aquí la segunda parte de su campaña de las mentiras y del miedo los particulares están protegidos por la ley cinco barra dos mil dieciocho y por más leyes y por el propio código penal y por la propia

lo sabrá usted mejor que yo seguramente pero claro ustedes

allí y no ni por la vía ni por ninguna de las dos vías

ni por la de la usurpación o la ocupación tampoco pero ustedes

viviendas que están protegidos por la ley los que no están protegidos si es lo que ustedes quieren cambiar pero no lo dicen son los grandes tenedores los bancos y los fondos de inversión pero eso se le olvida y ustedes bueno se abonan a las campañas de securitas direct e intentan meter miedo

decía la jueza natalia velilla que el tema de la ocupación es un ejemplo de alarma social creada artificialmente alentadísima por alguna prensa

me recuerda la época en la que todo eran mordeduras de perro a niños en los parques

de allanamientos de morada y el desalojo se puede producir en horas tras la detención

hay muy pocos casos en este país entonces le vuelvo a decir a qué juegan ustedes señores del partido popular y de ciudadanos le voy a repetir y lo ha dicho el señor fernandez de betoño es una muestra clara

la pobreza de aquellos que no pueden acceder a una vivienda

también política y económicamente entre otras cosas por las políticas de su coalición por ejemplo la flexibilización de la ley de arrendamientos urbanos la rebaja

tienen bastante que ver con los fondos buitre que han comprado miles de viviendas en el estado español que por cierto

lo hacen también porque saben que viene una crisis enorme y que los gobiernos el vasco y el español

por muy escudo social que puedan poner en marcha siempre va a hacer falta más y más porque la crisis económica va a ser enorme pero los grandes propietarios no tienen ese problema por lo tanto ustedes están defendiendo en este caso en esta iniciativa no a los pequeños propietarios sino tenedores y lo hacen nada más en un contexto de que quieren frenar los avances en materia de vivienda

del estado español ustedes suelen presumir de ser muy españoles y mucho españoles o eso decía un dirigente de su partido aquí tiene la constitución española y usted creo que se la conoce bien artículo treinta y tres punto uno se reconoce el derecho a la propiedad privada artículo treinta y tres punto dos la función social

delimitará su contenido de acuerdo con las leyes espero que también aplique ese artículo es decir la función social del derecho a la propiedad privada delimita su contenido y el artículo cuarenta y siete le recomiendo también su lectura y donde gobierne su aplicación

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada acaso

son menos españoles los que se ven obligados a entrar en una vivienda propiedad de un banco o de un fondo de inversión porque no tienen ingresos porque les han desahuciado o porque ha perdido el empleo y no puede pagar la hipoteca y se ha visto obligado a ocupar una vivienda propiedad de un fondo buitre o de un banco son menos españoles

digna para todos y para todas como dicen unos amigos míos menos susana griso y más belén

nuestra propuesta alternativa con todo el derecho del mundo venía a desarrollar la política

urgimos al gobierno vasco a desarrollar la ley de vivienda en materia de movilización de la vivienda vacía

del canon de la construcción de vivienda pública a destinar todo el presupuesto

nos vamos a centrar mientras además creo que tenemos que trabajar y creo que sería un buen acuerdo y le propongo si le parece bien que instemos al gobierno de españa en el congreso de los diputados a aprobar la prohibición de los desahucios

en definitiva no descansaremos hasta hacer posible la máxima de ni casa sin gente ni gente sin casa eskerrik asko eskerrik asko

buenos días la seguridad jurídica la propiedad y la libertad son bienes que se deben proteger no tiene sentido que haya fuerzas políticas que defienden a los que roban la propiedad de otros la lucha contra los delitos no es una cuestión de partidos sino de sentido común

a la guerra en ese sentido estamos de acuerdo en que las leyes deben garantizar un estado de las cosas tal

con un profundo respeto por la propiedad privada y es el estado el que debe garantizar esa situación sancionando a todo aquel el desorden que busque pisotear los derechos de los demás

que fomentan la ocupación a costa de una clase trabajadora digo trabajadora que paga religiosamente

el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental dentro de la democracia sin este derecho no existe ni el orden social ni la estabilidad económica

privada la ocupación ilegal de viviendas ha crecido un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años

la policía ha actuado en lo que va de año más de cuatrocientos once veces allí los vecinos de buena ley han renunciado a denunciar decía una vecina hace poco cuando pase algo gordo se acabará esto hasta entonces nadie nos hace caso estamos cansados

se ha convertido en un lugar de droga robos y problemas un gueto sin cobertura para los propietarios legales pero sí para los ocupas

sabemos que ahora van a echar a parte de estos ocupas deberían acercarse por el barrio para ver las caras de terror de los vecinos

es intolerable que una persona entre en la vivienda de otra la destroce y el legítimo propietario tenga que esperar años para recuperar su propiedad

a los ocupas hay que sacarles de casa en el mismo día que han cometido el delito y si cometen daños en la vivienda que luego no pueden reparar

nos encontramos ante una mafia institucionalizada que está cubierta a todos los niveles solo actúa la policía si se da

en las primeras setenta y dos horas algo que saben muy bien los ocupas

que viva de forma honrada si los delincuentes no se enfrentan a ninguna pena no ven que estamos lanzando un mensaje que nos lleva a la ruina nos complace ver que por fin el pp ha decidido tomar la iniciativa que no hace cuando gobierna lo podía haber aplicado de dos mil quince a dos mil dieciocho tiempo han tenido pero no les ha preocupado

a por el pan no pero irte una semana al pueblo y que te entren en la casa de eso qué dice la ley muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea en los últimos meses hemos visto cómo algunos partidos de la derecha y determinados medios afines a los mismos han optado por situar

discurso la ocupación ilegal de viviendas dándole una categoría de alarma social de problema social y contribuyendo a crear un clima de miedo y de inseguridad que no guarda para nada correlación con los datos disponibles

la proposición que hoy ha traído el grupo popular ciudadanos es claramente una búsqueda de convertir este parlamento en una cámara de resonancia del congreso

de explicar antes de nada y aunque parezca mentira qué delitos hay detrás del concepto de ocupación ilegal de viviendas y qué datos fehacientes y actuales hay al respecto para ello debemos diferenciar dos conceptos legales que se corresponden con la ocupación por un lado tenemos el delito de allanamiento de morada vivienda habitual o segunda residencia contemplado en el artículo doscientos dos

voluntad del poseedor en el que también se incluyen las segundas residencias en estos casos el desalojo es casi inmediato

del código penal ocupar un inmueble con violencia o intimidación pero que no constituya el domicilio o la morada

las usurpaciones que están produciendo sobre todo en inmuebles que son propiedad de bancos y fondos de inversión

del tiempo en la mayoría de los casos con un ánimo especulativo

en dos mil diecinueve se situó en doscientos treinta y ocho la más baja de los últimos seis años

la verdadera realidad la objetiva realidad que arrojan los datos y no la que ustedes de manera fehaciente señorías del pp y de ciudadanos quieren hacer ver

en cuanto al delito de usurpación la incidencia de este delito tuvo una probabilidad de ocurrencia del cero coma trece por ciento aproximadamente en dos mil diecinueve el número de condenas por este delito ha descendido hasta los cuatro mil seiscientos ochenta y siete casos

español siendo las comunidades más afectadas en el último periodo especialmente andalucía y madrid casualmente ambas gobernadas por el partido popular y ciudadanos en euskadi en dos mil diecinueve hubo

el uno por ciento del total de usurpaciones que hubo en españa por tanto del análisis de la realidad podemos concluir con fundamento que no existe un problema social significativo con la ocupación de la vivienda que constituyen el domicilio habitual y de segundas residencias

no están protegiendo suficientemente la propiedad privada hay que lanzar el mensaje contundente de que la propiedad privada está protegida también contundentemente por poderosas

no hacen falta más leyes lo que hace falta es una mayor ejecutividad en los tribunales que las aplican

llegar al proceso judicial se han llevado a cabo dos importantes actuaciones la primera la fiscalía general del estado ha publicado recientemente

en los casos de ocupación de inmuebles la segunda la secretaría de estado de seguridad perteneciente al ministerio del interior ha elaborado también una instrucción en la que se recoge un protocolo de actuación

las distintas iniciativas que están presentando el partido popular vox y ciudadanos concentran su atención en la ocupación por parte de movimientos organizados

y dejan de lado la otra dimensión la de la ocupación que se produce precisamente por la situación de mayor vulnerabilidad la de la necesidad

señorías además de no estigmatizar a determinados colectivos es atajar también la situación de desprotección y de vulnerabilidad en la que viven muchas personas que no han visto otra respuesta a su situación que la de ocupar

para tener un techo en el que vivir la impactante crisis generada por la pandemia que atravesamos va a agudizar otra vez por desgracia esta situación

años en los que mayoritariamente por cierto gobernó el partido popular se han practicado cuatrocientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y seis lanzamientos totales

han pasado a representar dos de cada tres casos en la actualidad dicho en otras palabras el dos coma tres por ciento de los hogares españoles han sido lanzados de sus casas en euskadi ese fenómeno ha sido afortunadamente muchísimo más limitado con un uno coma siete por ciento de todos los lanzamientos ejecutados en españa y el cero coma siete por ciento del total de hogares

no es ninguna casualidad repito no es ninguna casualidad que nuevamente

exista una relación causa efecto socialmente

ante lo que nos ha venido y sobre todo ante lo que nos puede venir con lamentable seguridad lo óptimo pasa por hacer mejores políticas sociales y de vivienda que nos permitan hacer frente a la vulnerabilidad de las personas

arbitrando alternativas y no la estigmatización de aquellos colectivos que son más vulnerables cosa que por cierto ustedes están muy acostumbrados

inmediato desplegando todos nuestros recursos para hacer frente a la crisis sanitaria

más acuciantes sobre las personas y hogares y seguramente por ello el gobierno central ha aprobado diversas medidas que buscan proteger a los arrendatarios y propietarios

por si acaso le hago un repaso muy superficial de ello

aplazamientos temporales y extraordinarios ayudas al pago de alquiler como los prestamos que están financiando con cargo al plan estatal de vivienda dos mil dieciocho dos mil veintiuno

de vulnerabilidad económica que necesiten financiación para el pago de alquiler moratoria de la deuda hipotecaria para aquellas personas que tengan dificultades para pagar la hipoteca a consecuencia de la crisis derivada de la covid hemeretzi

el gobierno vasco cuenta con políticas sociales y con un convenio del que antes he comentado sus bondades y que desde luego no voy a volver a repetir mire

me ha dado la sensación de que usted ha venido aquí y nada más salir a la tribuna lo primero que ha hecho ha sido justificarse justificarse

yo he traído una iniciativa y ustedes han traído una enmienda que nada tiene que ver

no mire señor gordillo ustedes han venido a hablar de ocupación

y han venido además a hablar de ocupación en los mismos términos que lo hacen en otras cámaras y especialmente en el congreso de los diputados y se han encontrado que ante su discurso nosotros hemos hecho una enmienda de carácter social frente a su estigmatización

para que aquellas personas que están sufriendo riesgo de vulnerabilidad o ya son por desgracia vulnerables tengan una alternativa habitacional para que puedan vivir techo me da la sensación que ustedes han traído con un caso concreto que usted además ha mencionado se han agarrado

una iniciativa que como le he dicho lo único que pretende es que esta cámara se convierta en una cámara de resonancia de sus discursos en el congreso de los diputados y me parece además de desacertado una buena manera de que usted nos haya puesto aquí la cuestión en suerte nada más iniciar su intervención se nos haya ido a tablas
lo que desde luego sin duda alguna es un auténtico error eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

bukatu zena orduan ere una proposición no de ley

urgente instemos al gobierno de españa a aprobar una ley que garantice el derecho a la propiedad y que combata la ocupación

se debería de plantear en el congreso de los diputados de madrid y no aquí y no décimos que no haya que garantizar el derecho a la propiedad pero

lo hemos hecho constar en el acuerdo al que hemos llegado el resto de los grupos de la cámara salvo

pues que también lo que tenemos que hacer es garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y combatir

una proposición no de ley en la que en su justificación no aporta ni un solo dato referente a euskadi en el que

números referidos a la ocupación ilegal de viviendas y no generar situaciones infundadas de alarma según el consejo general del poder judicial en el año dos mil diecinueve

en españa y según el instituto nacional de estadística en españa hay tres coma cuatro millónes de viviendas vacías un trece coma siete por ciento del total y son estas las que son susceptibles de ser ocupadas y aquí es donde habría que desarrollar también políticas públicas de vivienda para poder hacer que estas viviendas cumplan

que tienen que es la de que sean ocupadas legalmente por personas que necesitan una vivienda según datos del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana en españa hay cerca

residenciales y si se tiene en cuenta que el año pasado se presentaron

solo habría afectado al cero coma cincuenta y seis por ciento de esas viviendas

la cifra de trámites iniciados el consejo general del poder judicial habla de que solo habría afectado al cero coma dieciséis por ciento de las casas

entiendo que está claro dónde debemos de poner el énfasis y dónde debemos de actuar desde las instituciones uste dut arazo larria

el debate ha ido un poco por lo que comentábamos al principio nada nada nuevo bajo el suelo en cuanto a las posiciones por eso lo decía yo un poco también antes hay palabras aquí

que se los grupos suelen reaccionar cada cual en su ámbito con una inusitada virulencia dialéctica lo que pasa que hombre

los argumentos que aportan pues tampoco nos convence hay temas hay temas

la bancada tal tema de la ocupación las otras bancadas

es que hayan sido capaces y en eso les reconozco les reconozco la habilidad y le reconozco la habilidad señor andueza

no me libro tampoco de sus consejos e intentaré seguirlos perdóneme yo es que como no soy político profesional estoy todavía aprendiendo pero

porque ha conseguido atraer al partido nacionalista vasco hacia

a la que planteábamos nosotros sino que bueno si

nosotros hemos planteado esta enmienda porque realmente entendemos

esto es un tema que preocupa de verdad y nosotros creemos

no quiero aprobar muchas leyes y engordar el ordenamiento jurídico porque sí como por cierto se suele hacer en otros lugares sino que simplemente habría que cambiar algunos elementos procesales no quizá antes es que no se me ha habido perdone pero

las habíamos comentado las había establecido yo un poco en la defensa

pero bueno quizá cada uno venimos aquí a leer nuestro discurso y al final

pero en fin es un tema que preocupa y yo creo que preocupa de verdad y podemos mirar hacia otro lado pero la realidad en este sentido es tozuda entonces me hablaba no es que en euskadi usted tiene que hablarnos aquí solamente es que en euskadi los

es que uno ya sería demasiado me dice no es que se han inventado aquí le quitan a uno la vivienda por irse a comprar el pan que se lo digan a la señora de portugalete que se lo digan a bitori es decir claro sí hombre es que es así es que es así claro

pues entonces ya surgen los problemas y me extraña también esa vamos no me extraña viniendo de las bancadas

lo que suele suceder mezclar un poco todo no es que el artículo cuarenta y siete tal hombre sí por cierto la constitución que nos ha enseñado creo que está desactualizada le falta la reforma ciento treinta y cinco imagino que por eso la conserva porque tiene

pero en todo caso el artículo cuarenta y siete como usted bien sabe hay que interpretarlo de acuerdo con el artículo cincuenta y tres de la constitución que es el que establece que esos derechos los llamamos principios rectores de la política social y económica hay que interpretarlos de acuerdo con las leyes que los desarrollan artículo cincuenta y tres in fine que suele decirse pero bueno oiga pues

y yo le animo a que lo siga haciendo porque yo creo que es la que nos ha dado

yo vuelvo a insistir nosotros podemos estar de acuerdo en gran parte de las cosas que se han dicho respecto del acceso a la vivienda podemos estar de acuerdo

por cierto sin controlar los precios que solo ha servido para destrozar el mercado del alquiler eso por cierto lo de controlar los precios ya lo hizo franco y miren qué mal ha salido

esperaba este tipo de reacciones de los otros de los otros grupos

me ha sorprendido mucho el partido nacionalista vasco pero es un problema que preocupa realmente mucho a todos los vascos es un problema que bueno supongo

porque son pisos o inmuebles que pertenecen a los bancos pues quizá kutxabank donde usted tiene un cierto control o incluso otras entidades bancarias

de este aspecto pero en fin era un poco el debate que no ha sido debate que esperaba no obstante nosotros seguiremos trabajando desde otras instituciones también desde el congreso

y también por supuesto que se proteja el derecho a una vivienda digna a través de la actuación que tienen que hacer en este sentido los poderes públicos pero este señores era otro debate muchas gracias

eskerrik asko bueno le decía en la primera intervención es que usted

que utilice tengo una máxima que aprendí hace muchos años lo cortés no quita lo valiente

campaña que su partido junto al partido popular vox y

de la pobreza y de simplificación de un fenómeno que evidentemente es complejo pero también

si hay algo protegido creo que por las leyes es el derecho a la propiedad y ya lo hemos mencionado anteriormente la propia constitución española los artículos que hemos citado del código penal

respaldaron junto al partido popular y al pdecat entonces pues claro o

en consonancia y creo que además le hemos respondido con el desarrollo de políticas públicas con todas las diferencias que tenemos entre los cuatro grupos parlamentarios que hemos firmado esa transacción y lo voy a decir de nuevo o sea los derechos

al tema judicial es verdad que hay que mejorar la parte de la dotación de medios y usted creo que también está trabajando en ese tema del sistema judicial para donde se producen esos atascos corregirlos

que ustedes de una manera tan torticera manipulan y sobredimensionan tiene que ir pues parte por lo que hemos acordado los cuatro grupos que aprovecho para agradecer que hayamos

a ese acuerdo por el desarrollo de políticas públicas de la ley de vivienda de euskadi de la nueva ley de vivienda estatal y hablando de legislación o sea el partido con el que usted forma una coalición fue el bajó el tipo penal del delito usurpación o sea digo digo que usted quiere cambiar una ley que también

lo hicieron y hablando de ocupaciones a mí es verdad

del estado español pero creo que hay un tema que son responsables directos ustedes el partido popular ciudadanos y también vox que los apoya en la comunidad de madrid

de inversión y que hay una sentencia que obliga al uso y a su función

distintos portavoces hemos dado sobre los delitos de

seguramente con una sola firma no sé si de su vicepresidente aguado o de la presidenta ayuso pueden devolverles la función social para que reflexionen sobre ese tema y luego yo le animo también en euskadi cuando hemos hablado de

hubo uno por ejemplo entonces yo por ejemplo creo que hay otro problema mañana vamos a hablar de ello hay

no he visto ninguna iniciativa de su partido para defender a esas familias del cambio de condiciones de contrato

solo decir que por supuesto por supuesto que hay problemas de vivienda pero señores de la izquierda la ocupación que ustedes respaldan solo agrava el problema no lo soluciona trabajemos por una solución que garantice el derecho a la vivienda y que garantice también la propiedad privada

dicen que la ocupación ha bajado durante este año sí que es cierto

eskerrik asko mahaiburu andrea decía la señora martínez en su primera

en el que se produce el delito le puedo asegurar que el gobierno ha actuado un poco tarde pero en lo que a ustedes respecta

gordillo mire aquí no se viene a aprender

le tengo que reconocer que creo que ha sido muy injusto

usted sobre la política profesional mire si usted no quiere ser un político profesional puede hacer dos cosas primero renunciar a su escaño y segundo puede donar usted su sueldo el sueldo que se gana como parlamentario a cualquier entidad benéfica que seguro

que provocan reacciones airadas en determinados grupos en esta cámara entre los cuales

desde luego que nosotros reaccionamos y reaccionamos contundentemente frente a la desigualdad frente a la homofobia frente a la xenofobia frente a la injusticia

se lo puedo asegurar y hoy creo que lo ha podido usted comprobar mire nosotros aquí no hemos venido a hacer nuestro discurso

otra cosa es que a usted no le gusten las cosas que le décimos pero cuando usted

tenemos el derecho y en este caso la obligación de debatirla

lo que digamos y mire solo le voy a decir una cosa aquí

le hemos puesto unos cuantos argumentos encima de la mesa ha salido a la réplica

ninguno en cualquier caso mire creo que el señor

referencia a una noticia sobre

de ser adquiridas viviendas destinadas al alquiler social le voy a dar otro dato otra noticia del pasado diecisiete de octubre cuando un fondo buitre que tenía aproximadamente unas mil setecientos viviendas que por imperativo legal

al ayuntamiento de madrid sabe lo que le dijo la señora ayuso que no las quería que no las quería por tanto cuando vengan aquí a dar lecciones de no sé qué primero infórmense segundo

en ningún caso vengan aquí a hacer demagogia desde un buenísimo que desde luego desde ahora mismo le digo

hablamos de quince mil autónomos en la hostelería suponiendo y esto es un cálculo aproximado

sean ampliables partidas como la rgi que garantizan un derecho

que reúnan las condiciones para acceder a ese derecho pero si hablamos de mil autónomos y de una media de mil euros mensuales de ayuda podríamos estar hablando de otros quince millónes al mes

y seiscientos metros de tav mensuales para las demás bueno con cinco o diez kilómetros de tav